gehienbat ez dagoenean proposamen eraikitzaile seriorik bildu pretende erigirse en defensor de los colectivos que peor lo están pasando

hoy es el colectivo de personas paradas de larga duración además

único defensor de estos colectivos muy vulnerables frente a un gobierno inmóvil que no se preocupa por los mismos no es verdad en su interpelación reconocía que el gobierno ha puesto en marcha diversas acciones recogidas en el plan de empleo aunque le parecen insuficientes que se ha aprobado la rpt de lanbide también lo decía en la interpelación

contradice en parte por lo menos la acusación de inmovilismo absoluto que achacan al gobierno beraz nahiz eta zure gustukoak ez izan neurriak

langabezi kopurua bajatu hilabete honetan datu positiboa ere lo mismo que critican la inacción del gobierno y la falta de ideas cuando los datos son malos debieran tener la valentía de reconocer que algo tendrá que ver la labor del gobierno cuando la situación del desempleo va mejorando

superior a la media del estado que se halla en siete coma noventa y cinco por ciento

el saldo interanual muestra una disminución del desempleo durante ya veintidós meses consecutivos desde diciembre de dos mil trece con una tendencia cada vez mayor a ampliar la distancia con la situación del mismo mes del año anterior también

la mayor subida en diez años por lo tanto hay datos pequeños si quiere incipientes no suficientes todavía que permiten

respecto a las medidas concretas para los parados y paradas de larga duración hemos de decir que la problemática de este colectivo

a través de las distintas iniciativas medidas y programas puestos en marcha para crear empleo mantener el existente y mejorar la empleabilidad de las personas también por medio de la formación por ejemplo en el programa lehen aukera dirigido a primera experiencia laboral para la juventud jóvenes parados y paradas de larga duración aquellos menores de veinticinco años que lleven en esta situación un periodo de seis meses por otro lado señalar que todos todos los programas de lanbide priorizan la condición de parado o parada de larga duración a la hora de acceder

todas aquellas mayores de veinticuatro años y que se hallen más de un año como demandantes de empleo que traducido en euros

en cuanto a las medidas de inserción laboral ochenta y ocho mil trescientos doce personas paradas de larga duración han sido beneficiarias de estos programas

en los programas de formación para el empleo diez mil quinientos sesenta y uno personas desempleadas de larga duración se han beneficiado de los mismos habiéndose destinado ocho millónes

y respecto a los programas de inclusión social constan en lanbide cuarenta y uno mil quinientos ochenta y cuatro perceptores de rgi pcv que a su vez son parados de larga duración lo que supone trescientos treinta y dos millónes trescientos setenta y uno mil ochocientos euros en total constan

de larga duración como beneficiarias de los distintos programas de lanbide aunque es cierto que una misma persona

de programas de orientación y también recibir cursos de formación por lo tanto pueden estar doblemente en cuenta la suma total en euros asciende a trescientos setenta y dos millónes doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos euros

trabajando en la ilp sobre la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública creemos que

para analizar la posibilidad de introducir la exigencia de incorporar en determinados contratos la contratación de un porcentaje de parados de larga duración por eso en ese sentido era

horretatik ateratzeko el desempleo es una cuestión preocupante en todas las encuestas que se realizan es una de las cuestiones que más preocupa a los ciudadanos y también a los ciudadanos

duración porque además es un colectivo especifico es un colectivo que

es un colectivo que tiene especiales dificultades para luego incorporarse al mercado laboral y es más cuando más tiempo permanecen o permanezcan en esa situación de desempleo también lo tienen más difícil para incorporarse al mercado laboral por lo tanto es claro y obvio que es un colectivo junto a las mujeres y

en los que hay que incidir especialmente a la hora de promover diseñar políticas especiales dirigidas a la búsqueda de un empleo y a dar

como bien se decía en la interpelación en la contestación del consejero la comisión ha emitido una recomendación a los estados miembros para que los estados miembros implementen medidas adecuadas para lograr el objetivo de incorporar

parados de larga duración en ese sentido la comisión ha propuesto orientaciones con el objetivo de definir medidas concretas para este colectivo y sobre todo que estas medidas se encaminen a diseñar planes personalizados adecuados

personalizado también con acciones como decía concretas se nos decía el señor consejero que esta recomendación la lleva haciendo lanbide desde hace algún tiempo

en relación al fracaso o al no cumplimiento de los objetivos que ustedes se habían fijado en relación a las políticas de empleo es decir ustedes dicen que esta recomendación

por lanbide servicio vasco de empleo a través de acciones específicas eta ematen

no solo esto en relación a la recomendación sino como también tuvimos

ocasión de comprobar en la comisión de empleo y de asuntos sociales nos decía el consejero que

el objetivo de cinco por ciento en la intermediación laboral que era el objetivo que se habían marcado

más en ello pero sí que quiero dejar claro que lo que es evidente no está cumpliendo incluso reconoce su fracaso en el cumplimiento de los objetivos que se ha fijado en una materia tan concreta tan importante como es el tema de la creación de empleo de fomentar el empleo cuando encima tenemos herramientas propias

públicos sí nos gustaría saber ya al margen que se hagan afirmaciones de que no se van cumplir los objetivos

por qué no se cumplen los objetivos y que se haga también una evaluación de las medidas que se están

a poner en marcha programas por cierto algunos hay que decir que muy despacito señor consejero porque programas muy importantes porque programas locales y comarcales de empleo

con los ayuntamientos este grupo ha tenido que presentar prácticamente todos los ejercicios iniciativas porque las convocatorias o bien se retrasaba su resolución

la siguiente salía también con retraso es decir cuando pasamos a los hechos este gobierno no le acompañan los hechos

verdad presupuestar cantidades para todos esos programas que nos ha detallado

de estos planes de empleo que van dotados por cierto con veinte millónes de euros que están precisamente además dirigidos a colectivos con especiales dificultades como somos los parados de larga duración aquí ha habido iniciativas que le veo a la señora arregi que le veo que me niega con la cabeza aprobadas por la unanimidad de esta cámara excepto el partido

había que resolverla sin dilación y espero que ustedes aprendan de los errores y que en un mandato muy claro de esta cámara pues resuelvan y rectifiquen

también son colectivos concretos que ven como sus oportunidades de encontrar un empleo se desvanecen y muchas veces por la mayoría de las veces porque el gobierno no actúa con la suficiente diligencia

personalizados pero dónde está la evaluación de todo esto consejero porque a lo largo de esta legislatura a lo largo de estos tres años de legislatura que llevamos se han aprobado planes de empleo

y ahora se nos dice que no se cumplen los objetivos pero que hay que reforzar las acciones

de qué se está haciendo mal qué se están haciendo mal cuando no se cumplen los objetivos

de las actuaciones que ustedes ponen en marcha por lo tanto creo oportuna esta iniciativa nosotros no la enmendamos en un principio por coincidir

sí que tengo que comentar varias cuestiones en relación a la enmienda de transacción suscrita entre el partido socialista y el partido eh bildu

en un ámbito en que creo que ya no cabe la indefinición creo que ya no vale de hablar

a los hechos sí me hubiera gustado mayor concreción cuando se habla

pedimos a este gobierno que en dos meses presente en el parlamento una planificación una atención integral para estas personas con iniciativas concretas en mediación orientación y formación

que este gobierno haga una evaluación de todo lo que se ha puesto en marcha de los resultados y ver qué se está haciendo mal porque es obvio que algo se está haciendo mal

cuando hace referencia a dicha planificación que son los principales ejes de las políticas de empleo bueno en cualquier caso los vamos a apuntar sí que esperemos que como el consejero

nos analice claramente cual es la situación y cuales son las cuestiones que ustedes van a corregir en relación a esta cuestión que es absolutamente prioritaria desde luego para nuestro grupo

lo era para este gobierno pero a tenor de los hechos parece que no es la prioridad absoluta y espero señor consejero que se enmiende ya de una vez por todas la situación y esperemos que no sea ya demasiado tarde

y los acepto pero eso no cambia las cosas

esto es una realidad esto es una realidad solo desde la contratación pública con la incidencia que como hemos dicho tiene

dando lugar a través de cláusulas sociales que tengan en cuenta estos colectivos desfavorecidos que hoy hablamos de los parados de larga duración solo de esa manera

alguna oportunidad de trabajar ocasionalmente si acaso frente a una situación que se les antoja

de no más posibilidad laboral de no más trabajo es por una cuestión de decencia ustedes se han manifestado en contra

pero la cuestión es que nosotros proponíamos que se redactara un pliego de cláusulas administrativas generales para lo cual nos habilita

incorporar cláusulas sociales no hacía falta esperar a la ilp

que tendrá interés desde luego político ideológico a la hora de tratarlo pero cuyo resultado

pero esto otro sí que el gobierno lo podía haber hecho y haber incorporado cláusulas sociales para que porque además ese peso

es lo más interesante por lo tanto desde el gobierno vasco se puede arbitrar instrumentos para lograr que efectivamente

una mayor inserción de estos colectivos que tengan alguna posibilidad adicional porque verá nosotros por lo menos yo personalmente

yo de derrotas sé bastante y por lo tanto no sería cicatero con esa cuestión pero claro no alcanzar los objetivos cuando el gobierno mantiene una actitud que como se ha dicho por el resto de grupos pues en fin no parece gozar de gran nervio político

por esa falta de empuje y de nervio entendemos los datos que usted ha suministrado de lanbide pueden ser correctos pero como digo eso no cambia la realidad y nosotros creemos que

que como he dicho en la primera parte no tienen un correlato presupuestario eso lo puede hacer el gobierno para que el sector público vasco pueda incorporarlo a su acerbo de contratación

queda digamos a discreción de los órganos de contratación establecer en qué contratos o en qué porcentaje pueden incorporarse estos colectivos pero eso son medidas concretas eso son ya actuaciones prácticas realizables

y que al menos aunque no van a resolver el problema en su totalidad

que estamos en una sociedad que tiene en cuenta a estos colectivos por lo tanto nosotros creemos

en que hacer referencia efectivamente a lo de los planes comarcales

los planes locales y comarcales de empleo han llevado una suerte desigual nos parece muy importante el desarrollo local y los planes de empleo local y comarcal pero claro las agencias de desarrollo local que aquí han sido citadas ahora mismo como entidades colaboradoras y lo he señalado en la primera intervención en estos momentos no pueden llevar a cabo la orientación

el gobierno no tuvo la previsión de que en septiembre cuando vencían los convenios con las entidades colaboradoras tener ya previsto para entonces un decreto que permitiera

otro elemento más a los muchos que aquí van saliendo a lo largo de los debates

sobre lo cual es el impulso que el gobierno aplica a estas cuestiones por eso decía y no era una frase hecha las políticas activas para el gobierno son como un hijo no deseado realmente

que le vaya bien con el asunto porque claro es el elemento por el cual la oposición

hace reproche al gobierno por lo tanto no le viene bien pero luego desde el punto de vista de la acción política

programáticamente las políticas activas de empleo uno por uno pues en fin presentan déficit más que notables eskerrik asko itxaso jauna

badabil gobernua la tasa de intermediación laboral de lanbide en el año dos mil trece era del dos coma uno por ciento del dos coma seis por ciento va subiendo

lo óptimo evidentemente en la media de europa está en el cuatro por ciento y a lo que se comprometió el director de lanbide

de políticas de acción de empleo

un cinco por ciento al finalizar la legislatura todavía

un dos coma seis por ciento tenemos otras comunidades autónomas que han recibido

la competencia de las políticas activas de empleo hace mucho más tiempo que euskadi

en un uno coma dos por ciento madrid en un uno coma cinco valencia un uno coma cinco también nafarroa un uno coma seis que

pero seamos también realistas y saquemos la intermediación también los datos positivos que existen y que se va avanzando en esa

lanbide y también creemos que el hecho de que se haya aprobado la rpt va a afianzar todo el trabajo que se viene realizando en cuanto al tema de que tiene que ser algo personalizado

ya se hace que no sea suficiente que hay que incidir más de acuerdo pero ya se está haciendo desde que una persona acude por primera vez a lanbide se le hace una evaluación de empleabilidad y de aquí un plan individualizado a cada persona que acude a utilizar los servicios de lanbide por lo tanto por eso décimos que ya está haciendo el gobierno

no hubiera ningún parado de larga duración evidentemente pero las cifras y los números también hay que tenerlos en cuenta y estamos hablando de trescientos setenta y dos millónes doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos euros

personas paradas de larga duración partido socialista la verdad señora itxaso que usted no deja de sorprenderme

suficientemente despistado pero de repente hoy diceque sí que quiere que haga ese nuevo plan al que hace dos semanas pues mostró su rechazo

en cuanto al tema de los presupuestos evidentemente que era ese el segundo punto de la enmienda transaccional a la que han llegado bueno como ya le he dicho a la señora arrondo en mi primera intervención creo que no es el momento

y respecto al tercer punto que es el que usted recogía en su enmienda inicial y que recoge

le diré que nosotros votamos en contra y también el partido popular se abstuvo en aquella vez junto a upyd no sé lo que va a hacer la señora

se abstuvieron y le voy a decir en la respuesta que se nos envió ayer desde el gobierno en cuanto al grado de cumplimiento de las iniciativas parlamentarias

puede plantear serios problemas desde el punto de vista de su ajuste a la legalidad vigente y de hecho y esto para la señora pinedo que antes ha estado alabando lo bien que lo hacía la diputación

se halla doblemente recurrida ante los tribunales por la autoridad vasca de la competencia por un lado

por otro por lo tanto nos parece una auténtica irresponsabilidad el aprobar

sociales sí pero tampoco hace falta que esté incluido para que una administración si quiere lo pueda establecerlo allá donde tenga competencias lo pueden hacer

al gobierno si usted está tan preocupado por ello allá donde tengan responsabilidades de gobierno

señora garrido hombre le vuelvo a insistir creo que

no era el objeto del debate de hoy de los planes de la evaluación de eso ya hablamos en la comparecencia hace poco cuando vino el señor toña

a explicar los resultados finales de ese plan de empleo y previamente además había dado también en abril los datos provisionales por lo tanto creo

por lo tanto quizás tengan que variar ese apoyo a ese

no señora arregi no sé si no me ha entendido bien o igual no me he explicado bien

votar a favor de los dos primeros puntos aunque sí que hemos dicho nos hubiera gustado que hubieran sido más exactos y no tan inconcretos y nos vamos a abstener en el tercero porque el partido popular sí

y otra en la oposición como por ejemplo en el debate que tuvimos la semana pasada a propósito de las ayudas de emergencia social de que a pesar de su alcalde en el ayuntamiento de vitoria pide que el gobierno vasco ponga más dinero para las ayudas de emergencia social ustedes aquí le dicen que no es que eso es incoherencia señora arregi o también cuando ustedes están en la oposición

ponga más dinero pero bueno eso no es el tema el tema es que está claro que este gobierno no cumple los objetivos y no cumplir los objetivos no es una cuestión baladí

no se van a poder corregir los objetivos bueno también es cierto que parece que a veces entran en contradicciones pero también es cierto que también todo al final se ve

dónde los vamos a ver esperemos que esos ajustes desde luego no lleguen a esa toda retahíla de programas que usted nos ha relatado que no llegue a

locales y comarcales de empleo y que también se resuelvan este año con la celeridad que requieren

en el ejercicio anual como se ha quedado en este parlamento en numerosas iniciativas que ha presentado este grupo y a la que ustedes se han quedado solos

lo cual tiene su importancia que parece que por una parte también puede ser así a tenor de lo que ha reconocido el propio consejero

en marcha que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos que también hay de esto porque ya hemos visto que

no se están cumpliendo y eso que este gobierno su eslogan que lo tienen colgado yo creo en todos los sitios es que lo importante para este gobierno son las personas

que es el desempleo y una reflexión también a la que le tiene que llevar este gobierno cuando el propio consejero en una comisión de asuntos

problema señora arregi cuando ustedes no lo están haciendo bien hay una clara inacción una falta de diligencia pues las cosas

a esta cámara pero digo que para muestra un botón y para muestra el botón

diciendo que el problema de lanbide es que las empresas pasan de lanbide yo creo que eso es una afirmación que desde luego denota mucho lo que hay ahí en lanbide y la actitud

hace quince días isiltasuna mesedez

finalmente el que me contestó fue el señor erkoreka sobre cuál iba a ser el contenido de la próxima ley de transparencia

como dije en ese momento en el pleno de política general el propio lehendakari habló de transparencia

eran imprescindibles para el buen funcionamiento de una administración y para generar confianza a la ciudadanía y desde el grupo popular como dije entonces y lo reitero hoy compartimos sin duda esta afirmación y tenemos y créame señor erkoreka ya que está aquí que la preocupación es una preocupación honesta aunque usted

ponerlo en duda el otro día y nosotros también podríamos dudar en ocasiones del interés de este gobierno por la transparencia a juzgar por algunos hechos que ya dije en ese momento como lo relativo y quiero reiterar hoy aquí creo que ganaríamos en transparencia en lo relativo

sin embargo no está todavía vigente nosotros lo propusimos

barra ochenta y uno de gobierno para garantizar esa transparencia pero que todavía esa ley no ha sido esa

debatida y tampoco muestra mucho interés por la transparencia las resoluciones como decía

la comisión ética porque dicen de la credibilidad de la misma además de comprometerse a observar las previsiones de la ley estatal de transparencia lo que va de suyo nosotros creemos el lehendakari sí que puso de manifiesto que antes de finalizar el año el proyecto de ley de transparencia se iba a traer a esta cámara y nosotros lo que queríamos poner

es cuál va a ser el contenido de esta ley y si se puede ir más allá en dicho contenido evidentemente esta ley tendrá como objetivo

la posibilidad del escrutinio por parte de los ciudadanos de cómo se toman las decisiones en las instituciones de cómo se utiliza el dinero público o de cómo se actúan en esas mismas instituciones

es de suponer como no puede ser de otra manera que estas previsiones estarán recogidas

que el proyecto de ley de transparencia del gobierno era insuficiente para su aplicación en las distintas administraciones vascas señalaba que se quedaba en una extensión de sus principios

planteábamos en esa interpelación si el contenido esa ley de transparencia podía ir más allá

de esa ley se pueden incluir formulas para evitar una cuestión

y es el clientelismos político que en euskadi existe en los ayuntamientos en las diputaciones en el gobierno vasco y en las sociedades públicas

histórica y jurídica señalo que en nuestro interés se residenciaba en el aspecto jurídico fundamentalmente

hombre yo creo que el punto de vista antropológico histórico politológico del clientelismo político pues podrá estar bien para tesis doctórales

preocupa es el concepto jurídico de clientelismo político y como decía aquí y quiero reiterar hoy en muchas instituciones vascas

no tienen oportunidades porque parece existir trato de favor en las adjudicaciones públicas a favor de unas determinadas empresas que están siempre en manos de unas determinadas personas y esto como dije en esa ocasión no es algo

que lo haya oído es que me lo han llegado a decir a mí cuando les he preguntado porque no iban a una licitación porque no tenían y la respuesta era no tenemos posibilidades porque hay empresas mucho mejor posicionadas políticamente

una serie de preguntas retóricas preguntas que no se me contestaron si era casualidad que siempre las mismas empresas vinculadas

afines de un mismo partido político fueran las adjudicatarias en las contrataciones si era casualidad que

en el registro mercantil quién forma parte de esas constructoras aparecen cargos afiliados o afines al partido nacionalista vasco

se prestan servicios culturales servicios sociales siempre en muchos ayuntamientos será a empresas en cuyos cargos directivos aparecen cargos o excargos del partido nacionalista vasco

se dé ayuda a una empresa que entre en concurso de acreedores casi a renglón seguido y cuando uno ve a quién pertenece esa empresa pertenecía al señor ardanza

que las productoras que trabajan con e i te be también hayan estado relacionadas con cargos del partido nacionalista vasco o yo lo citaba aquí el caso del señor atutxa que constituye un autentico lobby

ekin y que en todas esas empresas aparecían hijos sobrinos

de quien fuera presidente de este parlamento y consejero del gobierno vasco

esas sociedades y empresas que resultan adjudicatarias en

vascas parece que la afiliación al partido nacionalista vasco y la afiliación

pues bien creemos que es necesario arbitrar medidas para que esto no suceda para evitar y también el clientelismo político porque aquí también en euskadi aunque algunos quieran venderlo como una arcadia feliz también ha habido corrupción pero lo que ha habido son muchos muchos ejemplos de clientelismo político para algunos ese clientelismo político es una forma de vida

en ocasiones las puertas entre lo público y lo privado sobre todo en un determinado partido político como yo decía aquí giran de una manera que lo que no se es cómo quienes están en esas puertas no llegan a marearse y como digo es necesario arbitrar medidas para evitar eso

parece que se ha aceptado porque hemos llegado a una enmienda

lo primero que hay que hacer es reconocer que existe que en euskadi existen muchos muchos casos de clientelismo político y que no es una práctica normal y que no se puede asumir como una práctica normal que no se puede asumir como algo normal que forma parte del paisaje que los cargos públicos del partido que gobierna en la mayor parte de las instituciones que es el partido nacionalista vasco que además se encargan de decirnos que gobiernan en la mayor parte de las instituciones verdad que esos cargos públicos que sus familiares que sus afines

monten empresas que luego sean a las que se otorgan las adjudicaciones de forma mayoritaria en esas instituciones eso

tenemos que cambiar esa filosofía que parece que aquí no solamente

también el mayoritario es siempre el partido nacionalista vasco es necesario que se pongan

medidas que se arbitren medidas para que esto no suceda y la ley de transparencia y buen gobierno es una buena oportunidad para

y parece que sí porque vamos a llegar a una enmienda en la que parece que sí que es el instrumento y también

que nosotros el grupo popular allí lo que propuso es que se arbitrasen una serie de medidas para evitar precisamente el clientelismo político lo que allí se dijo

se incluyese y por eso este grupo aquí aprovechó la situación de que se va a traer en próximas fechas una ley de transparencia para solicitar que como allí se había dicho que eso entraba dentro de la ley de transparencia

se arbitren medidas para evitar ese clientelismo político

una buena medida que nosotros no hemos puesto en la enmienda pero que se puede incluir y si no nosotros lo pondremos como enmienda cuando la

es precisamente que de forma clara como dije aquí se apareciera un histórico de los contratos que se han ido dando a las distintas empresas

están relacionadas y que todas aparecen en las mismas instituciones y quien forma parte de esas empresas

las luces rojas saltarían los ciudadanos tendrían muy claro aunque

muchos ciudadanos allí se vería la prueba

yo creo que esa ley de transparencia que va a venir a esta cámara es desde luego una buena oportunidad para que los ciudadanos conozcan cómo funcionan las instituciones

cómo tomamos las decisiones y dónde va el dinero público y cómo utilizamos el dinero público tendremos también oportunidad no sé si en esa ley de transparencia o si no a través

de verdad para garantizar el carácter intachable de todos aquellos que

los que forman parte de un consejo de gobierno y también será una oportunidad para cambiar esa filosofía política a la que yo hacía referencia

y para alejarnos de esas que no son ya sospechas sino de lo que es una realidad en euskadi que es precisamente la existencia de ese clientelismo político

propio de la ley de transparencia en nuestra iniciativa habíamos dicho que fuese la ley de transparencia y si no se considerase pertinente que se trajesen otras medidas legislativas que ayudasen a ello a través de otros instrumentos normativos finalmente creo que con la enmienda que hemos llegado puede ser de la ley de transparencia cuando se puedan recoger medidas y acciones dirigidas a combatir y evitar el clientelismo político también hemos incluido porque se hizo referencia aquí lo relativo a la modificación de la ley de contratos públicos que sabemos que

arbitrar medidas para evitar precisamente como decía aquí el señor erkoreka

que el clientelismo político o los conflictos de intereses existan también para garantizar el acceso a la información y que

solo tengan como excepciones causas muy justificadas y que en todo caso debe prevalecer el interés general yo

upyd como bildu creo que hay puntos interesantes creo que hay puntos que pueden convertirse

tramitando como pueden ser la modificación del e i te be o como puede ser el tribunal vasco de cuentas públicas

lo hemos incluido en la enmienda el tema del registro mercantil yo creo que son puntos interesantes pero creo son objeto o deben ser objeto de otro tipo de iniciativas y de otro tipo de debates porque aunque estén relacionados creo que si queremos precisamente incidir en el tema del clientelismo político esta iniciativa va dirigida fundamentalmente a evitar eso

que estén conectadas con esta y que pueden ser interesantes plantear desde luego nosotros estaremos dispuestos a debatirlas y a apoyarlas pero creo que

asunto muy determinado que es el que se ha recogido principalmente en la enmienda que finalmente hemos

grupo nacionalista vasco y nosotros mismos y que esperamos que cuenta con el apoyo de esta cámara nada más muchas gracias eskerrik asko

gracias presidenta el asunto que tratamos es de extraordinaria importancia la lucha contra el clientelismo dicho de otro modo la lucha contra la apropiación de las instituciones por parte de los partidos políticos o por parte de determinados partidos políticos para ponerlas a su servicio realmente estamos hablando de eso de la apropiación de las instituciones por parte de determinados

no es una filosofía como decía la señora llanos es mucho más es un modo de vida que hay que en fin

lo cierto es que la señora llanos también ha hablado de corrupción porque efectivamente esta todo absolutamente relacionado clientelismo amiguismo enchufismo

en los ayuntamientos en las diputaciones en el gobierno vasco en las sociedades públicas existen claros ejemplos de clientelismo político y efectivamente esto es así decía que parece existir trato de favor en las adjudicaciones públicas siempre de determinadas empresas que están en manos de personas vinculadas siempre o en el mismo partido político el partido nacionalista vasco y añadía que

para ser adjudicatario de licitaciones públicas de ayudas y de subvenciones

lo que la señora llanos proponía a través de su moción era perfeccionar en lo posible la ley de transparencia lo cierto es que el señor erkoreka aquí presente decía en aquella interpelación que no es el instrumento idóneo que la ley de transparencia no es el instrumento idóneo para abordar

administrativa ciertamente llama la atención que siendo esto así el grupo nacionalistas vascos haya presentado una enmienda remitiéndose a la próxima presentación de esa ley de transparencia porque el portavoz del gobierno vasco hace unos pocos días dijo que ese no era el instrumento

lo que ya sabemos y es que el partido nacionalista vasco no quiere luchar contra el clientelismo al revés quiere que ese clientelismo se mantenga para seguir sacando tajada política de ese asunto por lo tanto ciertamente llama la atención

erkoreka en aquella interpelación usted como es habitual manipuló claramente el debate y manipuló unas palabras de la señora llanos

en españa no se dan por contratar con los parientes y amigos usted manipuló porque la señora llanos

no planteó que las adjudicaciones públicas se concedan a amigos o familiares sino a cargos públicos o cargos orgánicos del pnv o a sus amigos o familiares que es parecido pero que es muy distinto usted con la habilidad que le caracteriza trató de manipular la historia no estamos hablando de miembros destacados o no destacados del partido nacionalista vasco que son beneficiarios de determinados tratos de favor o determinadas decisiones del gobierno vasco esa era la denuncia de la señora llanos

el clientelismo es el sistema de protección y amparo con que los poderosos

y de sus servicios el clientelismo político es un intercambio extraoficial

en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella a cambio de apoyo electoral efectivamente esto es el clientelismo político y en un sistema de clientelismo el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del estado

beneficio privado el patrón toma decisiones que favorecen a sus clientes y que estos compensan con la perpetuación en el poder del funcionario implicado

para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema resulta paradigmática a este respecto la habitual relación entre los principales medios de comunicación

y los principales partidos cercanos a cualquier de los más importantes organismos de poder fenómeno particularmente característico de sistemas con fuerte consolidación

de situaciones de bipartidismo de eso es de lo que estamos hablando y podemos poner casos muy concretos porque de qué hablamos cuando hablamos de clientelismo

o en alguno de los casos que voy a citar directamente de corrupción efectivamente estamos hablando de los casos apuntados por la señora llanos estamos hablando de ibarzaharra donde determinados cargos públicos presuntamente no trabajaban

estamos hablando de pinosolo caso de mala gestión y recolocación de determinados cargos públicos en determinadas empresas públicas estamos hablando de hiriko y el trato privilegiado a determinadas empresas estamos hablando del

estamos hablando del control también de los medios de comunicación públicos por parte de determinados gobiernos

y ocurre en otras comunidades autónomas esto también evidentemente favorece el clientelismo las corruptelas

por eso los partidos políticos por eso los gobiernos quieren controlar siempre los medios de comunicación para que no puedan destapar o denunciar todos estos casos hablamos evidentemente señor erkoreka de la compra de noticias hablamos de financiación ilegal de determinados medios de comunicación hablamos por pagar a determinados medios de comunicación para que estos medios de comunicación entrevisten a determinados consejeros del gobierno vasco

es clientelismo y hablamos también de la politización del tribunal vasco de cuentas públicas o de otros tribunales de cuentas lo cual impide lógicamente

en determinadas empresas y hablamos de los aforamientos es decir el trato privilegiado de los cargos públicos y hablamos de la politización de determinadas instituciones como el banco de españa como la comisión nacional del mercado de valores como los diferentes órganos reguladores de eso estamos hablando y estamos hablando evidentemente y esto tenía que haberse incluido en esa enmienda transaccional de la politización de la justicia en españa también estamos hablando de eso

tradicionales y mayoritarios en españa tienen la justicia colonizada a través del consejo general del poder judicial tribunal constitucional

la fiscalía y hablamos de las puertas giratorias y hablamos de los indultos a corruptos y hablamos del nepotismo y hablamos del saqueo de caja madrid o de bankia hablamos también del hecho cierto que

en su despacho esto es también una mala práctica política esto es también clientelismo esto es también trato de favor hablamos de la trama gürtel

hablamos del caso pujol o hablamos de los ere de andalucía y de tantas otras cosas de esto es de lo que estamos hablando y todo esto es clientelismo o corrupción en algunos de los casos favorece el clientelismo lo permite y desde luego no lucha

ley de transparencia sino que hace falta mucho más hace falta poner en marcha una batería de medidas para regenerar la democracia y luchar contra el amiguismo

y la corrupción política de ahí la enmienda presentada por upyd hemos tratado de recoger todo esto porque todo esto es necesario no es que sea interesante como decía la señora llanos es que es absolutamente indispensable una buena batería de medidas para regenerar la democracia en euskadi

hablamos de la apropiación de las instituciones por parte de los partidos políticos y de los poderosos para ponerlas a su servicio y todo esto hay que enfrentar esta es la batalla política que hay que llevar a cabo y que el stablishment trata de echar por tierra e impedir utilizando las vías imaginables para ello todo esto por lo tanto y mucho más debería hacerse para luchar contra el clientelismo el amiguismo y la corrupción ahí están todas esas baterías planteadas por upyd se trata de

de que haya más transparencia de que los medios públicos de comunicación cuenten y denuncien los excesos de los diferentes gobiernos se trata de profesionalizar los órganos reguladores

las instituciones se trata de garantizar una justicia independiente en españa cosa que a día de hoy no tenemos se trata de mejorar en definitiva

ahí están muchas de las cosas que deben hacerse y que los principales partidos políticos se niegan a llevar a cabo por eso la enmienda transaccional que ustedes han firmado
es claramente insuficiente para luchar contra el clientelismo las corruptelas el amiguismo o la corrupción eskerrik asko maneiro jauna

aspectos en relación no solo al clientelismo político sino a controlar los excesos que han venido cometiendo los partidos políticos que han gobernado para los poderes económicos también a la hora de legislar a la hora de cómo estos poderes se relacionan con el poder político

kostuak eta abar publiko egiten hasi ziren fueron los países anglosajones los que continuaron con esta tradición y si bien ni han desaparecido las corruptelas

por parte de los gobiernos podemos decir que por lo menos la capacidad ciudadana de tener acceso a una información más veraz más detallada y más cercana eso sí es algo real por supuesto que esto no aporta en sí mismo un bálsamo de mayor democracia ni de igualdad ni tan siquiera de mayor conciencia crítica con los excesos

los desmanes de las personas que toman decisiones en el sector público y de los grupos que gracias a su poder y a su dinero

esas decisiones puedan ir en una dirección o en otra y ante estas estamos

sino que esperemos que abra las puertas y ventanas de esos espacios oscuros del poder en donde campan a sus anchas los tiburones empresariales bancarios los moralistas escualos que hacen de la presión su profesión y consiguen así incidir en la política y en los grupos políticos

es que la ley designe como derecho fundamental el acceso a la información y se eliminen por ello aquellas excepciones que hoy se dan para no facilitarnos dicha información

o razones que puedan existir para no facilitarnos toda la información creo que no somos los únicos en esta cámara que defendemos hoy lo mismo aquí la segunda de la enmiendas es una enmienda que suma la original presentada por el grupo promotor de esta iniciativa

esto es la publicación sin censuras del registro mercantil con el fin de poner medidas contra las tramas societarias y acabar así con los conflictos de intereses con esta medida y abriendo la comunicación entre las diferentes administraciones públicas

como las que ha vivido perdón este mismo gobierno en relación a personas que estaban participando en los consejos de administración de empresas privadas siendo miembros del gobierno hubieran sucedido yo creo que el propio gobierno será el primero que esté interesado en que esta medida aparezca en la futura ley la tercera y última es en relación a los lobbies y grupos de interés como su existencia

deberemos empezar a regular la manera en la que se relacionan con la administración y con los administradores de lo público

por ello lanzamos esta idea al gobierno para que la incluya en su futura ley siempre que tengan a bien y les interese que la ciudadanía conozcamos con qué grupos de presión

y de qué hablan me imagino que así se nos aclararían las dudas que nos rondan por nuestras cabezas en relación al tav las incineradoras kutxabank

consultoras varias incluidas las de arquitectura auditorias varias etcétera etcétera etcétera en definitiva esto sería bueno para toda la ciudadanía aunque el más interesado seguro sería el propio gobierno como ven ustedes esta recomendación son en relación

y las bandadas de buitres que revolotean a su alrededor más concretamente alrededor del dinero público baina gardentasun legeaz

el plazo de aplicación para que las diferentes administraciones locales así es como ellos nos denominan

del partido de la corrupción el amiguismo y el clientelismo político esto no lo digo yo que también sino que las críticas a dicha ley provienen de la propia comisión europea

que realice un mayor control y que se refuerce el régimen de las sanciones esto es importante no solo para el pp sino para todos aquellos partidos que tienen unas líneas de financiación por parte de las empresas prestamos perdonados por los bancos donaciones de empresarios con contraparte posterior a nivel de contrataciones etcétera etcétera etcétera la segunda crítica que se hacía desde la comisión europea era que esta echaba en falta de esta ley de transparencia las garantías suficientes para la independencia de su mecanismo de control es el zorro el que sigue vigilando al gallinero

me imagino que esa designación a la comisión europea tampoco le hubiera gustado nada la tercera

de corruptelas en los sectores de la construcción y de la recogida de basuras

algunos en europa ya han puesto el ojo en lo mismo que les venimos denunciando nosotros y nosotras desde hace mucho tiempo la cuarta de las críticas sería de esta comisión se habla del coste de la corrupción en sí misma que la cifran en ciento veinte mil millónes de euros en definitiva una gran estafa realizada por grandes estafadores

existe la extrema necesidad de tomar cartas en el asunto y poner los medios necesarios para no solo ser una administración transparente sino ser una administración

y no como viene siendo hasta ahora una administración que beneficia ante los intereses de los partidos políticos y de los poderosos por todo ello

me congratula que la señora llanos haya sido permeable

que en su iniciativa parlamentaria de fórmula interpelación recibió del consejero de administración pública y justicia ya que en este momento la señora llanos no habla solamente de la futura ley de transparencia como instrumento eficaz

sino que hablaba también y abro comillas o en su caso de una normativa al efecto cierro comillas

al proyecto de ley de transparencia a la hora de evitar el clientelismo político pues bien hallada señora llanos

que el fenómeno de la corrupción no se puede abordar solo desde los parámetros de transparencia y buen gobierno las malas prácticas en materia de contratación pueden ser combatidas a través de la visibilidad de esos contratos

transparencia que es el objeto de este debate pero también y sobre todo

por eso está esa parte de la enmienda que hemos transaccionado que hace referencia a la ley de contratos y es la prevención el arma más eficaz para combatir las corruptelas y la corrupción

afloran en la fase precontractual en la fase de adjudicación y también en la fase de ejecución de los contratos pues bien este parlamento

relativas a la transparencia y también relativas como dijo el consejero

pero hay multitud de cuestiones que tienen que ver directa o tangencialmente con la corrupción política que están fuera de nuestro ámbito competencial

y también la que regula las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas

materias sobre las cuales el propio tribunal constitucional

de señalar su carácter básico comparto con usted la preocupación honesta que parece tener en relación con la mejora del régimen de control de la contratación pública y las medidas previstas para ello en la futura ley

que se está poniendo la venda antes que la herida ya que está prejuzgando un texto que desconoce usted sabe perfectamente que en efecto el gobierno vasco está tramitando este anteproyecto de ley pero sabe también que no se ha aprobado aun

los trámites para que el gobierno apruebe el proyecto de ley el proyecto de ley estará por lo tanto en la cámara en pocas semanas

cuando los grupos parlamentarios podrán debatir sobre las disposiciones que presenta la norma y donde usted

que el umbral de la publicidad activa en el ámbito de la contratación va a ser superior al establecido con carácter básico por la normativa del estado y superior también al conjunto de las comunidades autónomas y son la publicidad activa y el acceso a la información efectivamente los instrumentos que pueden contribuir a que el clientelismo político tenga dificultades para emerger y para desarrollarse pero como decía antes

tampoco seamos ilusos ya que por sí solos estos instrumentos no van a eliminar ni hacer desaparecer estas

prácticas pero en esta materia le invito a leer y repasar la normativa aprobada por comunidades autónomas gobernadas en su momento por el partido popular como castilla león y valencia le invito a cotejar esa normativa con la que traerá

y podrá comprobar que vamos a dar un paso adelante en esta materia vamos a ir más allá con una mayor exigencia que la prevista por esa legislación básica

yo le creo cuando el partido popular como partido popular usted dice tener propósito de enmienda

le creo y le quiero creer y también cuando dice que quiere incorporar medidas a la ley para limitar y para combatir

que no puede echar en saco roto las palabras del consejero erkoreka en sede parlamentaria hace dos semanas ni el compromiso del lehendakari y su gobierno

una ley edificante que a buen seguro servirá como modelo para otras administraciones públicas más si cabe

se ha elaborado sobre la base de incorporar muchas de las enmiendas que presentaron ustedes me consta que el gobierno está haciendo un esfuerzo

contra la ley de administración pública en este capítulo concretamente en el capítulo de información económica que tiene que hacerse pública y tal como lo comentó el consejero aquí se han aceptado cuarenta y tres enmiendas

se han incorporado quince enmiendas del grupo parlamentario popular que hacen referencia a la información relativa a la contratación por lo tanto en breve el gobierno traerá a esta cámara el proyecto de ley de transparencia participación ciudadana y buen gobierno del sector público vasco que es

sea acogida por los poderes públicos y la ciudadanía como un principio de actuación o un valor jarduera publikoko

berez gardentasuna bera ez da helburu bat la transparencia no es un fin en sí mismo como decía

el valor fundamental de la transparencia es su papel instrumental como herramienta de control del poder

puede erradicar su fortaleza futura pero para que alcance esa importante función se necesitarán quemar muchas etapas

a la madurez democrática de la ciudadanía y a un verdadero fortalecimiento de la calidad de las instituciones y de las personas que las pueblan algo tremendamente difícil a corto plazo todo es comenzar pero que nadie se haga grandes ilusiones

sobre una política que exige para su efectiva realización muchas cosas que aun no poseemos eskerrik asko eskerrik asko latxaga

muy bien gracias presidenta buenos días señorías el grupo popular nos proponía una ley nos proponía que la ley de transparencia cuya tramitación esperamos iniciar

y evitar el clientelismo político y nosotros estábamos absolutamente de acuerdo con ese planteamiento inicial como hemos manifestado en todas y cada una de las ocasiones en las que hemos venido debatiendo sobre estas cuestiones porque no es ni la primera ni será la última

porque de esto además como ustedes convendrán conmigo pues podemos hablar largamente los socialistas porque este es el camino señorías que iniciamos y en el que se avanzó a paso largo la legislatura pasada

el gobierno actual heredó el mayor avance en transparencia que se ha realizado en euskadi

irekia open data el perfil del contratante

una experiencia señorías acreditada y reconocida internacionalmente y por cierto sin ninguna ley por detrás que

avance incontestable que recibió del predecesor este gobierno

como herencia una mala copia de esa legislación estatal y vamos a pasar señorías lo he dicho muchas veces de la cabeza a la cola en materia de transparencia por eso señor latxaga mandamos al cajón esa ley que en fin ya nos ha puesto usted por

la venda antes de la herida no se hagan ustedes ilusiones y eso es muy peligroso pero mandamos al cajón como les decía ese proyecto porque

lo hemos dicho en cada ocasión que hemos tenido hemos apostado por una ley de transparencia radical porque esa transparencia de la actividad de los poderes públicos y porque el acceso a la información

constituyen señorías una de las principales exigencias de una sociedad democrática consolidada

exigencia en lo relativo a publicidad activa por la que los poderes públicos y no solo ellos sino también algunas entidades privadas que están subvencionadas públicamente o que persiguen servicios públicos vengan periódicamente a publicar de manera actualizada

y sobre todo estructuradamente todo el conjunto de la información relevante sobre su actividad funcionamiento y estructura y obviamente también estamos de acuerdo con garantizar el derecho al acceso a la información pública pues esto y no otra cosa son dos vertientes que de eso

que fundamentalmente consiste en considerar que todos los documentos son exactamente eso del público y por lo tanto no pueden ser retenidos más que para proteger

y como no podía ser de otra manera con el establecimiento de medidas contundentes señora llanos para evitar los conflictos de intereses sobre todo los conflictos de intereses económicos pero hay de intereses sociales que habría que ver me refiero sobre todo

de la creación de una especie de registro de intereses porque hay que recordarle por ejemplo en ese planteamiento que hace usted

declarar derecho fundamental al derecho de información que no especifica la doctrina acerca de este asunto aunque es obviamente conexa con otros derechos fundamentales recogidos en la constitución en el apartado de derechos fundamentales como puede ser el derecho a la participación política a la libertad de expresión y a la información veraz

ahora yo le tomo la palabra y además le invito a que en esa reforma constitucional que nosotros vamos a

y lo que haga sea trabajar con ahínco por el blindaje de todos los derechos fundamentales

lo tiene y también estamos en esa apuesta por la transparencia radical y creemos que eso también se tiene que traducir en una reforma integral del sector público que habrá de regularse por la ley ahora bien establecidos estos principios y estando de acuerdo

que ha traído a debate el partido popular hay que decir que echamos en falta en esta petición que no haya estado en la ley de transparencia que presentó el señor rajoy que pone muchísimas trabas para acceder a toda la información relacionada con los euros sobre todo con el dinerito público que manejan las administraciones y las empresas y sociedades públicas una ley que como le he dicho antes señora llanos

y lo digo por el gobierno de urkullu imitada pero a la baja en sus objetivos una ley que fue resignada y fallida hasta el punto de que carecía señorías como ustedes bien saben de un capítulo específico de régimen sancionador que es lo que hace

norma y que como les decía antes obligamos

expreso muy importante esto del mandato expreso de este parlamento para que le diera la vuelta

clara y eficaz para una administración moderna eficiente

nosotros creemos de verdad en la necesidad de una reforma integral del sector público y de la transparencia radical como principio básico de funcionamiento para el futuro porque los ciudadanos exigimos los ciudadanos exigimos

adecuada a las necesidades actuales que sea clara entendible clara en su lenguaje rigurosa que apueste por la evaluación de las políticas públicas en el inicio

que apueste por la evaluación de todas las políticas públicas que aporte valor económico y que sea transparente y que se pueda seguir sobre todo el rastro de cada euro público ese es uno de los núcleos importantes de esta cuestión seguir cada euro público seguir

que el gobierno se ha comprometido a traer y que esperamos que lo haga incluyendo las aportaciones realizadas

esperamos que una vez aprobada esta proposición no de ley que nosotros vamos a apoyar a pesar de que nos parece un poco más

más exigencia no exigencia radical menos

no medidas para eliminar en la medida de lo posible absolutamente todo este tipo de cuestiones y esperamos que esa ley que venga

reflejado en el texto que nos presenta todo esto que le estamos pidiendo

es un mandato parlamentario un mandato parlamentario de obligado cumplimiento porque esto es un acuerdo de todos y cada uno de los absolutamente todos los grupos parlamentarios

pero hay que decir que con independencia de que el grupo parlamentario que sustenta el gobierno efectivamente ha hecho una apuesta por todo esto que estamos diciendo esto

con la realidad porque parece una especie de buenismo declarativo porque

importantísimo a la información sobre contratos menores que ya ha denunciado este parlamento o también tenemos delante esa muy mala práctica de ocultar los órdenes del día de los asuntos de los que trata el consejo de gobierno que es asunto del que hablaremos más largo y tendido la semana que

yo creo que tendremos la ocasión de debatir esta ley y efectivamente como decía el señor latxaga pues tendremos la oportunidad de aportar cada uno de los grupos muchas cosas pero yo creo que el aviso de esa devolución de la ley de transparencia y de la ley reguladora de la administración pública vasca era un aviso importante

un texto el texto tiene que venir con todas estas cosas y esto es algo que hay que cumplir porque los mandatos parlamentarios a pesar de que luego celebramos sesiones

lo cierto es que hay muchas veces que pasan como los vencejos y no dejan rastro las palomas sí suelen dejar pero los vencejos no así que por favor

para que traiga una ley que sea contundente que apueste por la transparencia que apueste efectivamente por tomar todas esas medidas para evitar

y que traigan todas esas aportaciones nuestras aportaciones las del resto de los grupos parlamentarios y todas las mejoras en la línea que hoy se plantea
de momento quedamos a la expectativa muchísimas gracias eskerrik asko gallastegui andrea

gracias de nuevo señora presidenta bien por empezar

de las intervenciones la señora gallastegui pues yo estoy de acuerdo con muchas de las cuestiones que ella ha planteado aquí es verdad que si consideraba

matices no era muy contundente la iniciativa si hubiera presentado una enmienda para hacerla más contundente

también le admito esa querencia habitual del grupo socialista de hablar de debates del congreso de los diputados bueno

que se ha puesto del gobierno del señor lópez con relación al grupo

bildu yo no voy a descalificar como ha hecho

podríamos entrar a no debatir muchas de las cuestiones que aquí plantea muchas veces eh bildu si

todas las iniciativas en cualquier caso con relación a algunos

se podrán debatir cuando se debata esa ley de transparencia o la normativa que en su caso se tenga que hacer para evitar

de que lo presenten ustedes y en algunas cuestiones desde luego tampoco estén legitimados para hablar pero en fin

con relación a upyd si a mí me puede parecer muy bien todo lo que ha propuesto pero es que

de la democracia española y de la democracia vasca que vamos todo funciona fatal y es un edificio que se está desmoronando y creo que no es así en absoluto independientemente de que haya muchas cuestiones en las que se pueda mejorar

iniciativa no pretendo cambiar el orden constitucional y prácticamente mundial yo con que la ley de transparencia o si no y luego

no es el sitio adecuado otra normativa lo fuese que garantizase además de lo que tiene que tener

que se acabase con algo que aquí existe también que es la corrupción y el clientelismo político

con eso y de que es de lo que se trataba la iniciativa pues

que seguro que algunas están aquí además en trámite para que se aborden y que contarán con nuestro apoyo yo mire

que la verdad es que a pesar de que el señor erkoreka el otro día hizo un ejercicio de escapismo y un poco también como decía el señor maneiro

con esa habilidad de retorcer las afirmaciones que yo había hecho

y le voy a explicar por qué porque claro el señor erkoreka ya me dijo claramente

para nada ustedes presentan una enmienda en la que parece encima la hemos firmado una enmienda de transacción parece que sí que la ley de transparencia sí es el lugar o sí se pueden arbitrar medidas y ahora baja usted aquí y me dice no solamente

sino que encima no nos hagamos muchas ilusiones con la ley vamos

hombre yo ilusiones pocas ni muchas

no lo tengo tan claro el que ustedes reconociesen que aquí había clientelismo político y que es necesario combatir ese clientelismo político

aquí no pues no señor latxaga aquí también aquí también hay corrupción y usted me hablaba de que yo

porque les recuerdo el número dos de álava está implicado en el caso de miguel no pueden hacer política no pueden hablar

no es el y tú más que desde luego que no es edificante y que no contribuye a mejorar ni la política ni la imagen que los ciudadanos tienen de la política

el aquí no cuando aquí también como le digo aquí hay casos de corrupción y muchos muchos muchos

se trata de arbitrar medidas para que no los haya para que no los haya que dice usted que en otras comunidades autónomas

con los grupos políticos en esas comunidades autónomas y que allí también se propongan las modificaciones pertinentes yo estoy aquí
soy parlamentaria de la llanos anderea amaitzen joan sí voy acabando señora presidenta soy parlamentaria de la cámara vasca y lo que quiero es que en euskadi que hay muchos casos de clientelismo político

en ese clientelismo político el que aparece como beneficiado son cargos amigos familiares y no sigo con el resto de parentela del partido nacionalista vasco

que el gobierno vasco traiga esa ley y estaremos vigilantes si esto de aquí este propósito de enmienda era solo eso un propósito de presentar una enmienda para no quedarse solo o si realmente ustedes tienen la voluntad

del debate en euskadi hay clientelismo y corrupción política y ni el partido nacionalista vasco ni el partido popular quieren mover un dedo

anexo el partido socialista de euskadi tampoco esa es la conclusión del debate se plantea una iniciativa claramente insuficiente

al clientelismo lo dijo el señor erkoreka para hacer frente al clientelismo

no es el instrumento idóneo qué enmienda presenta el partido nacionalista vasco para luchar contra el clientelismo una relativa a la ley de transparencia conclusión no quieren luchar contra el clientelismo por qué porque ellos son los beneficiarios de ese clientelismo

y por eso el partido socialista de euskadi por mucho que hable a la vista de los hechos y de sus actuaciones políticas durante los últimos años es obvio que tampoco quiere mover un dedo porque hasta ahora no lo ha movido para luchar contra la corrupción política y el amiguismo en las instituciones vascas y españolas esa es la conclusión porque señores del grupo socialista qué van a hacer van a votar una transaccional que les parece claramente insuficiente

otra iniciativa que es mucho más clara y mucho más contundente qué es lo que van a hacer votar una transaccional que ustedes mismos han dicho que es insuficiente o rechazarla tanto que hablan y tanto que dicen hechos no palabras necesitamos

en fin nosotros hemos presentado una enmienda que seguro que es mejorable porque las iniciativas que se pueden presentar para acabar con todo esto son casi

pero desde luego ahí presentamos unas cuantas que vendrían muy bien para ser aplicadas cuanto antes por cierto para impulsar medidas de lucha contra la corrupción en defensa

a los países de nuestro entorno que hay cosas que las hacen muy bien

absolutamente nada lo que se pretende es engañar un poco a los ciudadanos hacer como que se hace algo pero igual si no cómo explican ustedes que no quieran incluir una referencia por ejemplo concreta que el derecho a la información sea

necesaria si no cómo explican que no quieran acabar con los aforamientos si no cómo explican que no quieran dar pasos para profesionalizar los órganos reguladores

y tomados a día de hoy por ustedes mismos si no cómo explican que no quieran despolitizar la justicia porque no les interesa luchar contra la corrupción porque ustedes son

hasta ahora no han hecho nada y a partir de ahora lo único que quieren hacer es hacer como que hacen algo pero sin tocar absolutamente nada si no por qué

por qué no piden que se despolitice la justicia por qué no incluyen la profesionalización de e i te be porque aquí evidentemente los medios públicos de comunicación tienen mucho que decir

insuficientes por qué no han mirado a otras enmiendas que hemos registrado por qué no han incluido algunos de sus puntos por qué

por qué van a votar una transaccional que no sirve para nada para taparse sus vergüenzas eso es lo que ustedes van a hacer por mucho que hablen

o de las propuestas que ustedes van a defender no sé exactamente cuándo para reformar la constitución española no palabras cuáles son los hechos no mover un dedo para que todo siga igual porque evidentemente ustedes no quieren acabar con casos como los de

la compra de noticias las puertas giratorias los aforamientos la politización de la justicia y tantas otras cosas hay tantas cosas por hacer

en españa durante los últimos años el partido popular y el partido socialista obrero español gürtel

los ere etcétera etcétera etcétera qué han hecho ustedes para enfrentar todo eso absolutamente nada

evidentemente yo no pretendo a través de mi participación en este parlamento

desde luego sí que se pueden poner en marcha una serie de medidas para regenerar la democracia para ensanchar la democracia para perfeccionar la democracia ustedes lógicamente no quieren mover un dedo porque ustedes son beneficiarios de ese clientelismo

se nos hablaba de que no hay que hacerse ilusiones y evidentemente que no podemos hacernos ilusiones ninguna además cuando vemos

que son los que firman esa transacción y son los ladrones los que

aquellos que nos traen a nosotros las soluciones ese es el ejemplo que

lo que no puede ser es que cada vez que a ese grupo se le puede llamar lo que sea

aquellos que hoy firman esa transacción no es inconcebible por todo ello

mesedez nos ha llamado cosas peores y no ha pasado absolutamente nada con lo cual pido que sea lo mismo para todos los grupos mesedez

bai vale decía que no nos podemos llegar a hacer ninguna ilusión

ni junto con el partido popular es quienes firman esta transacción

que si se identifican por algo uno en el estado español y otro en euskadi es por los casos de corrupción de clientelismo de amiguismo

ustedes representan todo eso y aunque no lo dejen decir en esta cámara tal y como pretendía la sociedad tiene bastante claro que ustedes

de toda la corrupción de todas las corruptelas y sobre todo de aquellas leyes que imposibilitan que se sepa la verdad esos son ustedes son los responsables son los culpables con lo cual ilusión ninguna

no puede haberla cuando alguien está exigiendo al partido del gobierno que hable sobre los casos de clientelismo como puede ser el caso ardanza el caso atutxa

porque saben ustedes perfectamente que no aspiran a sacar nada en claro de esta ley y hay otros grupos que sí lo intentamos

algo en claro porque ustedes no representan ni la trasparencia

nada ustedes representan lo más oscuro de la gestión pública ustedes representan lo más oscuro de la política y yo sí me veo legitimado tan legitimado por lo menos como lo está usted para hablar de lo que este grupo quiera

y si hay que llamarles a ustedes corruptos al partido popular se lo seguiremos llamando porque su acción y así se está demostrando incluso judicialmente es la de un partido
corrupto y se los seguiremos diciendo siempre eskerrik asko lópez de munain jauna latxaga jauna zurea da hitza

jardun publikoa el esquema del y tú más hace flaco favor a la actividad política sumida ya en el descrédito

si hay problemas busquemos soluciones sin olvidar que esas soluciones vendrán tienen que venir necesariamente de la mano de la política

quisiera hacer una breve referencia a algunos planteamientos hechos por el señor maneiro

el señor maneiro dispara contra todo y tira por elevación mezclando cuestiones que este parlamento tiene en su mano

cuando sabe o debe saber que es algo recogido en la ley orgánica

y es allí donde debería plantear las modificaciones oportunas habla también de justicia politizada de los órganos reguladores etcétera por cierto usted no tiene

pero usted no tiene ningún empacho en acudir de vez en cuando a esa justicia politizada

asimismo carga contra todos los ismos y no se refiere precisamente a fenómenos pictóricos

el clientelismo no sé qué más ismos ha dicho todos los demás ismos habidos y por haber y lleva usted un camino al estrellato como imitador del inefable también paco martínez soria en su papel de don erre que erre

usted siempre habla de lo mismo de su temas de sus temas sí

se hacen al respecto una serie de planteamientos maximalistas que curiosamente no fueron recogidos en la norma foral de transparencia de la diputación foral de gipuzkoa

curiosamente se limitó esa norma la norma foral hacer un corta y pega de la legislación estatal

bueno el refrán viejo castellano que dice consejos vendo pero para mí

me da la sensación de que no parece de que digan lo mismo cuando salen de la plaza salen del palacio aplíquense también ustedes el cuento

habla usted de que la transparencia sea reconocida como derecho fundamental

tienen que estar recogidos en textos de rango constitucional también habla de facilitar el acceso al registro mercantil

es un registro público qué pretende que el gobierno vasco facilite algún link no lo acabo de entender

porque recoge el concepto de que la publicidad activa y el acceso a la información pública

tenga dificultades para emerger y para desarrollarse pero en lo relativo a algunas acusaciones ya repetidas

por la señora llanos me voy a permitir a leer una nota de prensa y es del fiscal superior de justicia del país vasco

y dice que no habría investigación de oficio sobre empresas relacionadas con la familia del

y ex presidente del parlamento vasco juan maría atutxa y ha pedido al pp que

si tiene pruebas de que se han podido cometer irregularidades lo dice

no lo dice el partido nacionalista vasco ni el consejero erkoreka el partido popular

la pasada semana a la fiscalía vasca a que abra una investigación de oficio sobre la adjudicación de doscientos contratos públicos por un importe superior a sesenta y cinco millónes de euros que según ha denunciado se han realizado en los últimos años a empresas relacionadas con la familia de atutxa en una entrevista concebida a radio vitoria

que él actuara de oficio creo que la persona que dice tener esas pruebas

o al juzgado ha destacado en alusión

javier ruiz creo concluye el señor calparsoro que es un tema lo suficientemente serio

rodeado de publicidad tiene un rango importante para que las cosas se lleven a donde tienen que llevarse

si es que entiende que hay un delito con lo cual en esta materia los parlamentarios del grupo euzko abertzaleak nacionalistas vascos no vamos a recibir lecciones de ninguno de los grupos

gracias presidenta buenos días de nuevo señorías buenas tardes ya

señora llanos no se trata de ponerse medallas yo lo único que hago

la realidad es tozuda y la evidencia también yo solamente constato un hecho pero en cualquier caso

tantas cosas señor maneiro usted ha venido aquí y lo primero que ha dicho cuando ha intervenido es que el señor consejero cuando correspondió a la interpelación que le hizo la señora llanos utilizó un lenguaje falaz y además de manera torticera cambió los términos para decir una cosa que yo no había dicho y además aquello no era igual

un hábil aprendiz sobre todo de las cosas malas porque con una muy mala

no permitiéndole contestar a la señora llanos o a cualquier otro usted lo único que hace es poner en desvalor

es usted un parlamentario muy en fin digamos que no es muy riguroso no dice usted lo que tiene que decir lo dice simplemente al final para que nadie le pueda contestar y para hacer frente al clientelismo político y para regenerar la política y para regenerar la democracia hace falta políticos que vayan de frente y no como usted diciendo que los demás no tienen ni idea de lo que están haciendo y

de la democracia de lo mejor para los ciudadanos y sobre todo su programa electoral que la mayor parte de las veces por cierto lo bueno que tiene esta copiado

el reconocimiento del derecho fundamental a la información en esa modificación constitucional que vamos a tramitar

está pidiendo es irse y me parecería también importante

de intereses pero el problema está qué pasa con

o son también de carácter social porque yo estoy muy segura por ejemplo que habrá varias o muchas asociaciones o muchos grupos de presión

que igual no quieran reunirse con bildu o por lo menos no quieran

por lo tanto vamos a ser un poquito serios y yo le aconsejo parafraseando a

y vaya a limpiar su guarida primero y luego deje que los demás hagamos lo que tengamos que hacer

y finalmente al partido nacionalista vasco el tono que usted utiliza me parece muy razonable señor latxaga lo único que le quiero decir es que

y estoy segura de que así será porque yo creo que después de una derrota parlamentaria de este tipo en el sentido de decir oiga usted devuelvan esta ley

expreso que yo espero que se cumpla estoy segura que se va a cumplir

las leyes que vengan a clarificar el panorama político en relación a la transparencia y a la ordenación del sector público estarán mucho mejor de lo que estuvieron y ahí nos vamos a ver